efectivamente nosotros somos demócratas y ustedes no

hace un par de horas como demócratas de toda la vida y nos calificaba así de manera despectiva y efectivamente el resto de parlamentarios somos demócratas de toda la vida porque hemos defendido con argumentos nuestras posiciones políticas mientras que ustedes

no lo han hecho así y por lo tanto nosotros somos demócratas y ustedes no son demócratas y no podrán ser demócratas mientras no condenen a eta y no exijan a eta

y por otro lado hablaba usted de sabotaje y a día de hoy el mayor sabotaje que sufre la sociedad vasca es la existencia de eta que todavía no ha desaparecido y la negativa de eh bildu y servicios auxiliares

a eta y deslegitimar su historia ese es el mayor sabotaje

la sociedad vasca por lo demás señor lehendakari y en relación a lo que es la lucha nosotros nos remitimos a nuestros veinte principios que entregamos al gobierno vasco

en lograr la derrota definitiva e incondicional de eta sin ningún tipo de acuerdo ni negociación garantizar que no habrá ni un gramo de impunidad

deslegitimar a eta y su historia defender la dignidad

y de las víctimas del terrorismo defender los principios democráticos y como decía antes hacer justicia este es nuestro posicionamiento estos son nuestros principios no participaremos en ningún tipo de ponencia

y convivencia expresamente que no tiene otro objetivo que hablar de los problemas que tiene el mundo de batasuna básicamente presos y política penitenciaria por lo tanto me remito por no insistir a nuestros veinte principios que son

deben defenderse por parte de las formaciones políticas democráticas para alcanzar la libertad plena y la derrota definitiva sin ningún tipo de impunidad

por lo demás señor lehendakari efectivamente yo en mi primera intervención

insistir y señalarle a usted como el responsable último de las políticas que se aplican en euskadi de las decisiones que se toman

de lo que significa su figura y del propio autogobierno por eso yo he querido insistir en que es usted el máximo y por lo tanto no puede ponerse de perfil y por lo tanto ya digo un reconocimiento expreso de lo que significa su figura y de la capacidad del gobierno vasco para impulsar aquellas medidas que pueden ser muchas para cambiar la situación y salir de la crisis y garantizar la mayor

la actividad económica y la prosperidad y por lo tanto

a esto debería dedicarse usted tiene margen crisis económica paro desigualdad desahucios recortes

hecho uno estamos peor que hace nueve meses que es lo que usted ha venido a decir y es cierto estamos peor que hace nueve meses y yo le quiero llamar la atención su responsabilidad ante esta situación efectivamente euskadi no es en absoluto una isla decisiones que se han tomado en europa nos han perjudicado decisiones que ha tomado el gobierno de españa nos ha perjudicado hay una crisis internacional y por lo tanto y como consecuencia de eso

para impulsar esas medidas que nosotros consideramos

si no se aplican pensamos nosotros que no se va a salir de esta situación y que otra vez volverán los recortes sociales la precariedad

del desempleo usted y creo que sobre todo el señor lópez vienen a poner en valor su pacto

han firmado escuchándole al señor lópez digamos que viene a decir que con este pacto se van a resolver todos los problemas que existen en euskadi y yo lo que he venido a plantear es que tengo serias dudas de que esto efectivamente vaya a ser así

me he leído los compromisos que ahí se asumen me he leído los plazos en algún caso inexistente o incluso las medidas muchas inconcretas que se plantean

lo que significaría modificar el entramado institucional reformar la ley de territorios históricos o reducir drásticamente el sector público societario vamos a mirar al futuro efectivamente

vamos a ver en qué medida se toman esas decisiones y si finalmente tal como decía el señor lópez se hace todo lo que se supone que aquí se dice que se hará o más bien lo que el señor lópez dice

que han sido el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi los que han firmado este acuerdo y han introducido en ese acuerdo estos compromisos y teniendo en cuenta que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

nada para resolver estos problemas concretos me refiero al entramado institucional

comprenderá que tengamos serias dudas de que efectivamente vaya a ser así en todo caso ya digo lo iremos viendo señor

señor lópez lo iremos viendo veremos si en los próximos meses o años se produce descoordinación fiscal

es en este parlamento donde se decide la fiscalidad para los ciudadanos vascos tal y como planteaba el señor lópez nosotros pensamos que no va a ser así desgraciadamente en lo que se refiere a la reforma fiscal no me voy a parar en ella debatiremos sobre la materia

reconociendo que tiene avances en todo caso ya digo que la próxima semana

veremos si efectivamente este pacto propone y lleva a cabo la reforma de la ley de territorios históricos que nosotros consideramos absolutamente imprescindible

y en los próximos años de momento ya digo que en ese documento se concreta nada más ponencias nuevos informes en fin nuevos plazos pero en definitiva posposición de las decisiones que deben

básicamente en estos meses no se ha hecho nada señor urkullu por mucho que usted lo repita se ha hecho mucho menos de lo que puede hacerse

y veremos en los próximos meses qué es lo que da de sí si se produce una reducción drástica del sector público societario o no teniendo en cuenta que ustedes crearon

y que el partido socialista la mantuvo durante los últimos tres años y medio pues lógicamente comprenderán ustedes que nosotros no nos fiamosmucho y por eso

más bien creemos que se trata de un pacto que trata de salvaguardar sus intereses de partido en todo caso ya digo

nuestra misión y nuestro trabajo aquí es ser vigilantes y recordarle a usted el máximo responsable de las políticas que se aplican en euskadi creo que esa es y creo que debería centrarse en todo esto ya digo para reducir el paro para fomentar la actividad económica para salir de la crisis en lugar de plantearnos nuevos estatus con el único propósito de alejarnos de españa y de europa nos parece una muy mala idea en todo caso nosotros estaremos ahí que no en silencio sino hablando muy alto para defender más igualdad

más unión y menos desunión y le digo lo que le decía al principio vamos a defender en este asunto nuestros principios el derecho ha decidir

la consulta es inaceptable no se puede fraccionar el censo electoral y la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos españoles esto es lo que vamos a defender frente a sus posibles ansias

como le digo más unión más igualdad menos desunión y menos desigualdad concéntrese en lo importante concéntrese en lo importante y olvídese de nuevos estatus para alejarnos de españa

gracias señora presidenta lehendakari en esta intervención

ahora me ha dicho que yo le echaba en cara que ustedes solo habían

aprobado en consejo de gobierno proyectos de uno que sí llegó a este parlamento

y usted me ha interpelado de alguna manera y como usted sabe

las leyes en elaborar esos proyectos de ley que vengan al parlamento como si

y usted sabe que eso no es así porque mire usted que se ha dedicado en su discurso en varias veces a hablar del entorno y que le gusta tanto mirar a ese entorno

y mire galicia elecciones a la vez que el país vasco en estos nueve meses han elaborado diez proyectos de ley

y tengo una lista de por lo menos cinco comunidades autónomas más que en ese mismo periodo de tiempo han podido traer a sus parlamentos

y siete proyectos de ley no es diferente no es diferente no es diferente es que hay voluntad de traer y hacer

lo que estamos midiendo hoy aquí de lo que estamos hablando lehendakari es de lo que ha hecho este gobierno

usted viene aquí a decirle a los ciudadanos qué es lo que ha echo durante nueve meses y qué es lo que va a hacer en el futuro y yo me pregunto

en qué ha cambiado su situación de estos nueve meses anteriores a ahora

le ha cambiado que ha traído aquí un pacto un pacto que mire después de todas estas horas

de fuera los ciudadanos que nos estén siguiendo este debate estarán muy confundidos aquí hay un acuerdo

no le he visto poner en valores acuerdos sino más bien pasar de puntillas al que sí le he visto

lópez que ha bajado aquí hiperventilando con este acuerdo porque no venía a hablarnos a nosotros venía a hablar mirando a madrid porque está en otra situación pero aquí estamos para hablar de cuál es la situación de euskadi

a eso hemos venido por lo menos desde el partido popular a hablar

pero claro usted no puede evitar el mirar a su entorno y entonces nos habla del gobierno de mariano rajoy para diferenciarse

yo le aseguro yo le aseguro que ni en el peor de los casos mariano rajoy se hubiera imaginado que hubiera tenido que tomar las medidas que tuvo que tomar y ustedes lo saben y ustedes lo saben

tomar en concreto la decisión de subir impuestos pero tuvo la valentía

entre otras cosas porque también aquellos señores de allí con su política económica

no nos podemos quedar solo en el momento en que lópez coge

claro porque sería hacernos trampa porque ibarretxe dejó un agujero de dos mil millónes las cosas yo creo que también hay que ser justas y decirlas

pero estamos en el momento en el que estamos y vuelvo a repetir lo que he dicho esta mañana vuelvo a repetir lo que he dicho esta mañana quién nos ha visto y quién nos ve

deuda endeudarse y mire usted me dice ustedes son de alguna manera responsables de ese endeudamiento

ustedes saben que nosotros limitamos la capacidad de endeudamiento ustedes lo saben pero es que fíjese lo que le quiero decir

que según usted nos han dejado en una malísima situación son los mismos con los que usted ha pactado la política económica es que en eso está basado su pacto porque luego hemos hablado de pacificación y no están de acuerdo en nada hablamos de autogobierno tampoco

a dónde nos lleva yo entiendo que usted se sienta muy incómodo en este pacto sí yo sé que se siente incómodo

a usted le incomoda y no está siendo sincero usted sabe que está incómodo señor lehendakari porque usted está diciendo

que con esa mayor recaudación que usted sabe de dónde va a salir que usted sabe de dónde va a salir y no de donde están diciendo va a reactivar la política económica me puede decir me puede decir de esos sectores que dice que usted va a reactivar es decir supongo que se está refiriendo a empresarios pymes

qué están diciendo de esta reforma fiscal dígame quiénes usted sabe qué le están diciendo de esta reforma fiscal si usted lo sabe no nos hagamos trampas en el solitario y usted me dice que este pacto está abierto

no nos hagamos trampas yo por eso le pido liderazgo

los ciudadanos de esta reforma fiscal que han entendido perfectamente de dónde van a salir los recursos de esa vaca que

que ya no daba para más por cierto bien callado que está

ya nos gustaría escucharle ya nos gustaría escuchar qué piensa del pleno de política general que vamos a tener el próximo veintiséis ya me gustaría muy callado está nosotros le estamos ofreciendo y se lo he dicho un acuerdo

entre muchos pequeñitos entre gobiernos pequeñitos unidos entre todos podemos avanzar

le unimos además el gobierno de españa y la capacidad que tiene en europa es que entonces si nos podríamos plantear

de todo dirigente salir de esta crisis en la cabeza no en la cola y lo que ustedes están planteando con esta reforma fiscal

es que no es creíble que usted nos dé cuatro datos señor lehendakari para decir que vamos a crecer que por cierto otra cosa es curioso que cuando vamos del ebro hacia arriba o del ebro hacia abajo las cosas nos parecen distintas con cuatro indicadores que usted nos ha dado tenemos que efectivamente ya estamos posiblemente

mariano rajoy hace poco dio por lo menos tres indicadores más positivos y el partido nacionalista vasco le decía que no eran suficientes para creerse que realmente estábamos saliendo de la crisis otra cosa

el partido popular tiene que tomar decisiones presupuestarias recortes cuando es el partido nacionalista vasco ajustes y rigor presupuestario vale le acepto pulpo como animal de compañía

no es justo porque usted sabe lo difícil que son tomar decisiones en estos momentos y me parece de una frivolidad absoluta que usted esté comparándose con el gobierno de españa sabiendo la situación

a la que ustedes han heredado mire rápidamente algunos aspectos el copago mire si son tan sociales elimínenlo

es jugar a lo que están jugando o estamos o no estamos pero esto no vale porque no cuela y si no explíqueles

alguna de esas medidas impopulares que se están tomando en el gobierno de madrid pero por favor seamos coherentes seamos valientes y digamos a los ciudadanos la verdad en cuanto a las aes las ayudas de emergencia social señor lehendakari

en la legislación pero son importantes son muy importantes y ustedes como bien ha dicho la primera iniciativa que presentaron en la legislatura anterior fue la que se diera

ahora es distinto ahora ustedes saben que están dejando a miles

desprotegidos y lo saben miles ayuntamientos que tienen que cerrar la persiana porque no hay ayudas esos

eso es un gobierno social en cuanto

yo sigo sin aclararme lehendakari usted dice que pertenece al partido nacionalista vasco y que por tanto tengo que entender que lo que buscan

la independencia bien pero usted aquí luego

que no se ha reformado entonces qué estamos es que aquí nunca se ha planteado una reforma estatutaria

y lo saben perfectamente señor lehendakari no nos hagan trampas no nos hagan trampas en cuanto señora presidenta voy acabando dos temas últimos en cuanto a eta

le tengo que decir lehendakari que usted de una manera inconsciente sigue manteniéndose en la equidistancia usted cree que como lehendakari puede venir aquí y decirnos

el dolor del pnv y eso con qué lo contrapone es que no es así

es que eso es lo que tenemos que cambiar es que usted sigue en esa equidistancia que se completa con lo que ha dicho el señor egibar sobre la humillación

en la humillación no le he entendido bien la humillación de quién de las víctimas ah era la humillación de los otros la de las víctimas no cuenta ahora entendemos lo que ha pasado con la txupinera pero es que ese es el problema

que en eso es lo que nos tenemos que poner de acuerdo que no puede haber equidistancia que ese es el error y termino

yo sigo pensando en el acuerdo en ese acuerdo que es posible sé que las diferencias hoy parece

insalvable pero estoy segura de que podemos encontrar puntos de encuentro con el partido socialista de euskadi y puntos de encuentro con el partido nacionalista vasco le pido liderazgo le pido liderazgo y vamos a caminar todos juntos gracias

intervenciones cruzadas a mí también me gustaría responder algunas de las cuestiones que se han planteado en esta

empezando por el representante de upyd al que únicamente le quiero dar las gracias por la defensa que ha hecho del acuerdo

bajo la apariencia de la crítica ha acabado diciendo que en este país hay que hacer todo lo que aparece en el acuerdo justo todo lo que el acuerdo dice que hay que hacer y se va a hacer gracias a ese acuerdo porque usted hablaba del parlamento que va a debatir y a acordar léalo que dice que lo ha leído léalo las líneas básicas de la política fiscal ya está

va a ver interconexión informática gracias a ese acuerdo habla de la reforma de la lth para le dos mil quince

acuerdo habla de la reducción de la administración y del entramado institucional está contenido en ese acuerdo es verdad es un acuerdo de política con mayúsculas de esa política transformadora al servicio de la sociedad y de la gente no va a resolver todos los problemas de euskadi

pero apunta y va a llevar a la practica muchas de las soluciones muchas más de las que existían hasta ahora gracias a la señora quiroga

porque este es un acuerdo lo he dicho para euskadi y para la sociedad vasca si yo miro a madrid a dónde mira usted con esas ganas locas que tiene de aparecer en la foto del acuerdo

claro solo una cuestión porque aparte de ese arranque furibundo que le ha dado de foralidad en esta tribuna

porque luego no se comparece nada con otros discursos que tienes a la revés bastante contradictorio pues ha entrado en el asunto otra vez de las políticas fiscales o de la reforma

y dice ser modernos en la escasez ya sabemos qué significa esto cuando lo dicen ustedes ser modernos

ustedes mantienen los privilegios muy bien solo para algunos la reforma fiscal que pretendemos lo que quiere es acabar con esos privilegios

porque claro a quién afecta el tipo del cuarenta por ciento del irpf que ha puesto rajoy a rentas entre

nosotros hablamos de más de noventa y uno mil a quién afecta el copago farmacéutico

a quién afecta la subida de las tasas universitarias un sesenta y seis por ciento

la reducción de las becas la supresión de las ayudas a las compras de libros las tasas judiciales los recortes y la privatización en la sanidad

no verdad a esos lo siguen protegiendo ustedes reparten muy bien

y para otros los sacrificios efectivamente rajoy ha sido un valiente pero esos valientes ya los conocemos el valiente que es

y el valiente que se achanta ante los poderosos y ante los que más tienen eso es la valentía que ha demostrado rajoy en este país

dos cuestiones en las que comparto el enunciado y la frase

usted dice y además ha sido central en su discurso que la economía no puede disociarse

que tiende hacia la independencia y yo a soberanía compartidas en las que incluso cedemos soberanía

claro que la economía no es independiente de la soberanía por eso me debiera de explicar con qué economía

porque hay un déficit entre lo que aportamos y lo que recibimos este año solo de novecientos millónes de euros y con la población tal y como va

con qué economía vamos a pagar las prestaciones del desempleo en euskadi con qué economía de dónde íbamos a obtener los recursos cuando

de dónde íbamos a tener los recursos para hacer política en este país cómo íbamos a pagar las infraestructuras del estado esa parte de la deuda que a usted le escandaliza que se ha contraído precisamente para hacer cosas aquí o infraestructuras aquí qué íbamos a hace fuera del euro

cómo nos enfrentamos a la globalización de la economía con esa soberanía exclusiva y excluyente

porque efectivamente la economía no es independiente de la soberanía por eso yo digo cedamos soberanía para tener una europa diferente capaz de controlar la

sobre la soberanía de lo pequeño no no la pregunta es dónde está la soberanía de la política

y eso necesita ceder soberanía a instituciones superiores para de verdad tener capacidad de influir segunda cuestión o segunda frase que comparto después de eso que dicen ustedes que todos son inmovilistas menos nosotros dice

que la democracia es que asuman lo que digo yo y dice no y lo dice con énfasis y me parece

espero que lo tenga íntimamente interiorizado espero que lo tenga radicalmente interiorizado

tan cierto que algunos hemos arriesgado la vida en este país para sostener ese principio

que ha querido que todos pensáramos igual que ha asesinado a los que pensábamos diferentes es radicalmente

por eso la democracia es incompatible con la violencia es incompatible con la justificación de la violencia es incompatible con la cobertura política a la violencia algo que ustedes siguen manteniendo en su lenguaje

usted no ha desmentido que justifique

cuando asesinaba precisamente a los que pensábamos diferente mire uno no es demócrata porque diga que es demócrata

porque se comporta como tal con todas las consecuencias cuando asume los principios los valores y las normas de la democracia y a eso estamos esperando yo no quiero cerrar puertas a ninguna

en el sistema democrático eso es lo que estamos esperando desde hace tiempo

recoger ese camino joseba egibar hacía una pregunta que era muy curiosa

y por qué no hace cuatro años o sea que soy yo el que ha venido a decir en esta tribuna que el mundo empezó

o han sido ustedes los que permanentemente han estado negando incluso que existiera casi crisis y que hicieran falta acuerdos hasta que ha llegado este gobierno por qué no hace tres años y medio cuando el anterior gobierno planteó estos mismos asuntos encima de la mesa

por qué ustedes bloquearon cualquier posibilidad de entendimiento sí

que gobernaban ustedes si se prestaron a hablar de la reforma fiscal o cerraron o bloquearon el asunto porque yo sí que puedo poner

o de los confesionarios oscuros o de que esto de que paguen más quien más tiene es solo pura demagogia

un solo concepto una sola propuesta en la que los socialistas hayamos cambiado desde que estuvimos en el gobierno

los mismos contenidos por qué no hace tres años y medio o hace cuatro años que también vivía este país

incluso peores que los que hay ahora por qué no el adanismo quién lo ha puesto

segunda cuestión dice que el estatuto sigue sin cumplirse de acuerdo y vamos a hacer entre todos que se cumpla ahora qué es el estatuto para usted solo un listado de transferencias

es autogobierno es marco de convivencia es pacto entre diferentes claro sí sí

mejorando estos tres objetivos y estos tres principios el autogobierno la convivencia de los diferentes y el pacto entre distintos si ponerse de acuerdo entre iguales está muy bien es muy fácil pero tiene muy poco valor político y social lo importante es ponerse de acuerdo entre los diferentes

político jurídico un marco de convivencia yo nunca he dicho que haya ningún texto inamovible

ninguno lo único sagrado para mí y para los socialistas vascos es la convivencia de los que pensamos y sentimos de manera diferente

en este país lehendakari ya hemos tenido el debate que teníamos que tener

y sobre lo dejado de hacer ahí están los datos ahí están las realidades son tozudos y nos dicen que no son buenos los datos reconozco que no van a mejorar por mucho que usted y yo

mejorarán si nos ponemos de acuerdo para hacer cosas que puedan dar respuesta precisamente

dos partidos distintos con un acuerdo que va a tener un gran impacto en las políticas del gobierno en los presupuestos y por lo tanto en las medidas que se van a poner en marcha para dar respuestas y ayudar a nuestras empresas a nuestras familias a las personas que lo están pasando mal en esta situación lo decía antes y lo repito si uno mira lo que está pasando a nuestro alrededor

cuáles son las noticias con las que uno se desayuna cada mañana

entre la política y la ciudadanía el acuerdo que suscribimos en euskadi es la mejor noticia política

en mucho tiempo la política con mayúsculas que se pone de acuerdo para resolver problemas no que siguen la bronca para crearlos la política con mayúsculas que tiene utilidad poniéndose al servicio de la sociedad porque efectivamente

para dar respuesta a los problemas de la sociedad la política como valor social

le decía que no conozco textos inmutables pero sí convivencia sagrada en ese sentido le ofrezco la vía vasca

la vía vasca de la suma de esfuerzos la vía vasca de una euskadi hecha entre todos para salir de esta sin dejar a nadie

sin marginar ni excluir a nadie de su propio país para conseguir una euskadi más moderna

más sostenible y más competitiva ese es nuestro compromiso que queremos compartir con todos y por eso vamos a seguir trabajando con la mano permanentemente tendida

bai erantzungo diot berari de eso estoy hablando estoy

hace falta la soberanía precisamente para no estar en esa disyuntiva que planteaba el señor lópez cómo pagamos las pensiones esa no es la pregunta la pregunta es quién decide cómo se pagan las pensiones porque hay otras maneras de hacerlo

que es contratar a una serie de personas expertos en seguros que por supuesto la mentalidad que tiene un seguro y lo sabemos todos nunca te van a dar más

porque la empresa tiene que hacer negocio y contratan una serie de expertos en seguros y todos ellos dicen que no podemos dar más de lo que recibimos

porque la caja de la seguridad social está un poco escasita los únicos que no coinciden con ese criterio son precisamente unos pocos expertos que no son expertos de seguros aquel planteamiento no es pagamos según recibimos de la caja de la seguridad social el planteamiento

es un derecho al que hay que responder y se puede hacer el pago de las pensiones en base a una contrapartida presupuestaria y no necesariamente

ay y si nos vamos qué hacemos con las pensiones qué hacemos con los pobres jubilados

planteatzen denean un setenta y seis por ciento del presupuesto

claro si estuviesemos hablando de un gobierno soberano seguro que no era el setenta y seis por ciento estamos hablando de un gobierno que tiene un presupuesto para una serie de competencias concretas es decir no podemos

del setenta y seis por ciento que emplea el gobierno vasco en políticas sociales a lo que sería un setenta y seis por ciento de un presupuesto de un pueblo soberano

no podemos hacer esa transpolación de ninguna manera mesedez isiltasuna

para que no se confunda ni de legislaturas ni de cifras

que es cuando entra el gobierno lópez con el apoyo del partido popular el remanente de tesorería es de seiscientos veinticuatro millónes y la deuda

y en diciembre del dos mil doce esa deuda se multiplica por nueve y pico

y la capacidad de endeudamiento que tienen todas las administraciones evidentemente

en lo que se refiere o casi nulo en lo que se refiere a este gobierno se ha hablado de fiscalidad y yo voy a aprovechar también

la rotonda de quién pregunta a quién porque en la euskal bidea nola

las cifras son las que son señor lópez si coge usted dos mil diez dos mil siete o me coge la última década dos mil diez dos mil once

de veinticinco coma cinco en seguridad social le voy a hacer una pregunta

se está metiendo ya la mano al fondo de reserva en el estado

en tres días porque no supera los sesenta mil millónes

que existen los datos de pirámide de edad incluso de pensión media por qué regla de tres va a ser viable si el sistema de pensiones se nutre de la aportación de los cotizantes españa que tiene diez once puntos más de paro que euskadi por qué regla de tres me quiere explicar a parte de ser una previsión estatutaria

ahí está la parte del incumplimiento del estatuto de autonomía la gestión

estatutaria que es tanto tanto como todo el presupuesto del gobierno vasco cuentas públicas la inversión pública

vascas el estado al que se ha referido usted invierte el cuatro por ciento a duras penas somos el seis

todos los años ese diferencial se está ahorrando el estado no invierte aquí no invierte aquí no es corresponsable ni siquiera en su participación

eso se le olvida decir a eh bildu porque está en otra rotonda y la fiscalidad las previsiones que se hacen el debate que todo esto se podía haber hecho con anterioridad

tenía ya formulada desde la noche electoral cuál era la coalición que quería o el apoyo parlamentario que quería para su gobierno lo definió lo decidió y tuvimos una reunión me acuerdo

aquí no es cuestión de personas no es cuestión de si ibarretxe o no ibarretxe ninguno del pnv va a ser

y no voy a seguir en las aportaciones ideológicas del presidente del partido socialista esa era una operación política por la que apostaron ustedes y ahora han cambiado de registro

de registro han pasado de la relación que mantenían no tan efímera como algunos han publicado con eh bildu en fiscalidad a decir

eso es lo que ha ocurrido eta vamos a la euskal bidea nik

atentzioa deitu bai esaten du ahora sí por fin ha llegado la hora de euskal herria y uno se pregunta coño ahora sí por fin ha llegado la hora de euskal herria

qué ha pasado qué ha pasado para que ahora se decida que ha llegado la hora de euskal herria es que eso es pensar y actuar

como si el mundo arrancara con uno mismo y cuando

toda la sociedad todo el mundo tiene que girar entorno a esa estrategia eso es una equivocación y además del análisis

que produce una parálisis parálisis política

por supuesto en el terreno de las responsabilidades políticas que cada cual tendrá que asumir

asequible y sano pero es que a mayor abundamiento cuando

se introduce una iniciativa muy concreta porque gure bidea o euskal bidea es una cosa pero es que el año pasado en el debate de política general en gipuzkoa se presenta una iniciativa por bildu

la verdad es que la atención fijada a ver en cuál es la respuesta o el desarrollo de la pregunta porque

por parte de bildu con nuestra abstención porque queríamos ver exactamente qué es lo que hace la diputación de bildu no impedimos sino que dimos paso la pregunta es

y se aprueba hoja de ruta hacia la independencia

y nosotros por aquello de que no sea que nos encontremos ya en la antesala de la independencia hemos dicho

cómo ve esto la diputación o qué desarrollo ha hecho del tema o de la encomienda

si alguna parte se segregara por la vía correspondiente uno se pregunta pues habrá alguna vía